gracias presidenta proponen ustedes recuperar la ponencia que ustedes llaman

y la convivencia en primer lugar ustedes pretendiendo engañar a la ciudadanía llaman al foro

y la convivencia ante este hecho cabe recordar por un lado a los proponentes de esta iniciativa y en general al conjunto de la cámara que no estamos en guerra y por otro lado que la convivencia no es otra cosa que el estado de derecho a la legalidad vigente empezando por la constitución española en segundo lugar debemos decir muy claramente que esta ponencia parlamentaria no tiene como objetivo ni la derrota incondicional y definitiva de la banda terrorista eta ni la deslegitimación de la violencia tiene como objetivo hablar de los asuntos que interesan a la llamada izquierda

el objetivo es hacerles la rosca el objetivo es hacer que todos asumamos sus problemas el objetivo es que todos asumamos su agenda y nosotros lógicamente no estamos de acuerdo upyd

creo que claro y coherente en este asunto dijimos que no apoyaríamos

que tuvieran como objetivo fundamental hablar de lo que interesa a batasuna o resolver sus problemas es decir no vamos a asumir dócilmente su agenda ni sus reivindicaciones históricas justo lo que ustedes hicieron

cuando vuelven a proponerla no somos los demócratas quienes debemos acercarnos a las posiciones de los que siguen sin respetar la democracia

nuestra legalidad vigente nuestro estado de derecho y nuestra democracia

no hay que caminar por caminos que discurran fuera de la normalidad

no debemos asumir como propia la agenda de eso que se llama izquierda es decir no hay que hacer lo que ustedes hicieron al constituir esta ponencia ni hacer lo que ustedes insisten en hacer al proponer ponerla nuevamente en marcha esta ponencia como ustedes saben perfectamente no tiene otra función ni otro objetivo que hablar de aquellos asuntos que interesan a la llamada izquierda

la excarcelación de los presos supuestamente enfermos de eta la flexibilización de la política penitenciaria que afecta a los presos de eta y obviamente mezclar a las víctimas del terrorismo con otras supuestas víctimas para mezclarlo todo y apuntalar la falsa teoría del conflicto político es decir ustedes proponen que los partidos políticos nos reunamos todas las semanas para asumir como propia la agenda

es curioso que ustedes pongan tanto empeño en impulsar esta ponencia para hablar de todo lo anterior

para aclarar los trescientos veintiséis crímenes de eta pendientes de resolver es ciertamente curioso es decir ustedes proponen que hablemos

por mucho que sus representantes políticos aquí presentes se muestren hoy críticos o disconformes con las características de esta ponencia en el fondo

no hay que inventarse caminos que discurran fuera de la normalidad democrática nuestras obligaciones como representantes políticos y como representantes de los ciudadanos son obvias defender la legalidad vigente y el estado de derecho y proponer cada cual las reformas legales que considere

y taquígrafos para que quede claro la única paz que quiere upyd

y la democracia no hay nada nuevo que inventar por lo tanto nosotros votaremos en contra de su constitución y no participaremos nosotros nos negamos

a la teoría del conflicto político según la cual en euskadi existieron algo así como dos bandos enfrentados cada uno de los cuales provoco víctimas

una falsa teoría del conflicto político que nosotros no vamos a fomentar ya digo upyd no quiere fomentar esa mentira por lo que les dejamos a ustedes

esaten duena eta defendatzen duena no hay que inventarse nada extraordinario para deslegitimar el terrorismo se defiende la legalidad vigente se defienden las instituciones democráticas se defiende la dignidad de la ciudadanía y se defiende la dignidad de las víctimas del terrorismo es decir se defiende todo aquello que eta pretende destruir y se defiende que los criminales cumplan las penas impuestas en lugar de buscar cómo reducimos sus penas o los sacamos antes

aún y en esto deberíamos concentrarnos en lugar de confraternizar con quienes se niegan voluntariamente a condenar a eta o en lugar de asumir sus problemas como si fueran nuestros alguno se preguntará quizás y luego de que hayamos logrado derrotar a eta

luego nada luego seguir defendiendo la legalidad vigente y el estado de derecho sin cesiones ni cambalaches de ningún tipo

si no había que darles nada porque mataran mucho menos porque dejen de hacerlo o se disuelvan si es que esto ocurre alguna vez ya hace un año planteamos

conocidos para oponernos a la constitución de la ponencia y para negarnos a participar en ella hoy nos ratificamos en los mismos argumentos

la cosa se agrava en esta ponencia participará eh bildu formación política que sigue sin condenar el terrorismo y que defiende la equiparación de víctimas

que defiende la impunidad y que defiende la teoría del conflicto político y que defiende los intereses políticos de eta una razón añadida

y no participar en esa ponencia nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

señorías bien en relación con esta cuestión mi grupo no apoyará la enmienda de transacción que firman el grupo nacionalista y el grupo socialistas vascos y no lo hará porque no se dan las condiciones objetivas mínimas para constituir una ponencia que se denomina

se situé en esa ponencia sin haber cumplido un requisito básico un mínimo ético que tiene que ser exigido como

para trabajar en ese foro parlamentario y ese requisito ese mínimo ético no se da y ustedes señores del partido nacionalista vasco y del partido socialista no se lo exigen nosotros sí se lo exigimos lo consideramos imprescindible y entendemos que por esa razón no tiene sentido hacer hoy

de paz y convivencia un grupo parlamentario de esta cámara se niega a condenar el terrorismo se niega a condenar los crímenes

y se niega a pedir su disolución y además por lo que ha dicho públicamente eh bildu

cómoda con la actitud poco exigente de ustedes firmantes de esta iniciativa no parece este el mejor camino en el que instalar unas bases de trabajo en igualdad de condiciones algo importante falla por un lado falla su exigencia señores firmantes de la iniciativa

la falta de respuesta ética de otros participantes y es que hoy no se puede apoyar y constituir esa ponencia sin constatar que supone un retroceso político un retroceso democrático

que nos proponen apoyar no es avanzar en el acuerdo alcanzado en la legislatura anterior es ir hacia atrás la izquierda abertzale presente en esta cámara hace un año dio un paso que tenemos que reconocer importante

claro y sobre la base de la condena del terrorismo se constituyó la ponencia que de alguna manera tuvo un liderazgo incluso en la persona de aintzane ezenarro miembro de la izquierda abertzale y su búsqueda de un acuerdo mínimo

que reconocer pero hoy no hoy hay un marcha atrás

se refugia en las posiciones conservadoras tradicionales de batasuna y el partido nacionalista vasco y el partido socialista no son capaces de sacudir ese inmovilismo

están como aprisionados en un estéril voluntarismo pero no son exigentes para qué vamos a crear pues una ponencia de paz y convivencia

ponencia del proceso de blanqueo y acomodo de bildu porque no va a ser un ponencia sincera y efectiva de paz y convivencia con las premisas con las que vemos que va a nacer y si nos olvidamos de la exigencia

entendemos que retrocedemos y ese lujo hoy en esta cámara

que no se lo puede permitir la asignatura de la paz y la convivencia es esa

no es la política penitenciaria ni la actitud de los demócratas ni nuestro entramado político institucional la asignatura pendiente es que eta desaparezca para siempre que su actividad criminal sea denostada por todo este parlamento y por toda la sociedad esa es la asignatura y señores del partido

no son ustedes exigentes en esta iniciativa y en este camino a seguir en este momento nosotros veíamos el otro día con estupor la posición de bildu recogida por un medio de comunicación eh bildu elogia que se baje el listón para encauzar la ponencia de paz nosotros no vamos a bajar el listón señor pastor

el listón ustedes garantizan que con esta iniciativa quienes hoy no lo hacen van a renunciar a su apoyo a eta y a su existencia o a sus actuaciones

un foro de confusión de pérdida de referencias de disolución de la exigencia vuelvo a repetir lo decía el portavoz de mi grupo hace

anteriores lo decía el señor damborenea y lo decía muy claro y por lo tanto nosotros estamos dispuestos a que sea una ponencia abierta abierta a todos aquellos que condenan expresamente el terrorismo de eta si no se deslegitima

después de cincuenta años aguantando el terrorismo de eta qué vamos a hacer en una ponencia sobre convivencia si eso no sirve para deslegitimar el terrorismo de eta si no sirve para deslegitimar socialmente ese caldo violento que se ha generado durante esos años en este país es evidente que no cumplirá sus funciones y decía él también y repito

como sí teníamos sí tenemos garantías de que eso puede ir en alguna dirección nosotros vamos a votar a favor de la ponencia

no se dan no se pueden identificar desde luego señor pastor señor iturrate no se pueden identificar esas garantías hoy está contaminada esta ponencia por la falta de exigencia del partido nacionalista vasco y del partido socialista vuelvo a decir

pero habría que ser más exigente con esa actitud de bildu

en ese sentido nuestro grupo va a mantener su posición en relación con lo ya planteado nosotros votaremos en contra

no entendemos que vaya a cumplir sus fines mi grupo

exigibles como yo lo he explicado mi grupo sobre la base de la constitución y que se podía trabajar en ello planteó en su momento una enmienda de totalidad a la planteada por ustedes nosotros

en la pasada legislatura y la condena del terrorismo y eso tenía que quedar bien claro con el objetivo de buscar de forma activa y pública la disolución definitiva de eta deslegitimar de forma pública conjunta la actividad terrorista del pasado

y que dirija la solución de las consecuencias del terrorismo desde la aplicación de la justicia es decir lo que habían presentado ustedes inicialmente más la condena del terrorismo

básico hoy está claro que ustedes han renunciado a ese pronunciamiento con su enmienda o lo que es lo mismo han renunciado a describir y a firmar unas condiciones mínimas básicas para dar respuesta a las necesidades de convivencia que eta

nosotros votaremos negativamente a la iniciativa que ustedes nos presentan muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

el reconocimiento del daño causado y de la dignidad de las víctimas todas ellas merecedoras del derecho a la verdad la justicia y la reparación y ni una sola causa política

de la ética y el respeto a los derechos humanos los derechos humanos constituyen un absoluto ético por encima de cualquier causa cuál de estos principios señorías resultan inaceptables para cualquiera de nosotros qué reparos podemos poner

estos principios señor maneiro no pretenden engañar ni engañan a nadie son claros y rotundos esas son las exigencias que los firmantes de la enmienda y ustedes también señor barrio cuando aprobaron las conclusiones de la ponencia en julio pasado fijamos como base

para el trabajo futuro en este parlamento yo entiendo que ustedes estén obsesionados por mirar por el retrovisor para que upyd no les adelante por la derecha

para que usted no pueda asumir en el día de hoy estos principios como exigencia básica cuando ustedes

este es señorías el suelo ético mínimo para avanzar queda mucho por hacer efectivamente y muchos consensos nuevos que construir pero serán sobre esta base

primero completar un relato clarificador de la violencia de eta así como de todo el resto de vulneraciones de derechos humanos y de sus efectos en los últimos cincuenta años

los procesos de reparación a las víctimas segundo impulsar y complementar en distintos ámbitos procesos y políticas de humanización

y la desaparición de toda forma de violencia o vulneración de derechos humanos y tercero promover una nueva cultura de convivencia y reconciliación social

sitúe la defensa de la dignidad humana en el primer lugar del orden de valores por eso la enmienda original que en su día presentó el partido nacionalista vasco

pretendía mejorar la propuesta inicial fijando un mínimo de ámbitos sobre los que se deberá avanzar en la ponencia no pretendía ser un listado cerrado

y normalización política de la ciudadanía vasca por tanto

transado con el grupo socialista con la voluntad de facilitar los consensos en esta cámara consensos que a la vista de los escuchado parece que no van a ser posibles en un inicio pero al que no renunciamos

la ponencia necesariamente deberá ocuparse de elaborar consensos preventivos en materias especialmente sensibles

convivencia y reconciliación hacer seguimiento e impulso de las políticas públicas en materia de memoria reconocimiento y reparación a las víctimas elaborar un dictamen con recomendaciones consensuadas sobre política penitenciaria e impulsar las políticas públicas de promoción y difusión

estas son las propuestas que el partido nacionalista vasco llevará a la ponencia estas y no cualquier otras

de los deseos o de los objetivos del partido nacionalista vasco como el señor maneiro puedan plantear estas son las que va a llevar el partido nacionalista vasco a la ponencia

trabajar sobre las que traigan el resto de grupos a la misma lo haremos con el mismo espíritu

la negociación el trabajo discreto y paciente

así hemos ido construyendo hasta el momento las políticas de memoria reconocimiento y reparación a las víctimas así vamos a continuar es la mejor garantía de que los avances serán firmes y protegidos del rifirrafe partidario

memoria memoria begi bakarra una memoria tuerta una memoria sorda una memoria desmemoriada

todavía hoy hay una presentación del señor amedo en los tribunales de bilbao

hoy no sabemos quién disparó a un aficionado del athletic cuando estaba con sus amigos celebrando la victoria todavía hoy tenemos lagunas inmensas en este país sobre la impunidad del estado que tenemos cero detenidos sobre todas las violaciones y sobre todas las impunidades y todas las conculcaciones de derechos

muchos pero ustedes están planteando una memoria tuerta sorda y desmemoriada

ustedes están planteando una parte

ha ocurrido han ocurrido muchas cosas y voy a decir más tenemos que hacer en tres fases la creación de la paz la construcción de la paz hay que mirar al pasado

de una memoria que tiene verdad justicia y reparación no una memoria como he oído antes que luego viene

mire señor maneiro lamento decirle que no me ha sorprendido su

porque su intervención viene motivada probablemente más por una postura ideológica de su formación política que por un afán sincero

y la convivencia es decir la intervención de manual que esperábamos todos de usted yo no renuncio de todas formas a que ustedes también cambien evolucionen traten de ser siempre más firmes que el partido popular en estos asuntos que parece que es una obsesión de ambos

de racionalidad como el que yo espero que el partido popular haga en el futuro porque mire señor barrio nosotros no hemos rebajado ninguna exigencia ética nosotros décimos claramente en la transaccional que la ponencia de paz y convivencia se constituye para continuar los trabajos de la ponencia anterior porque entendemos ha diferencia de bildu que la ponencia anterior ha existido y ha habido un trabajo intenso representando a una inmensa mayoría de este parlamento que ha llegado a unas conclusiones finales que nosotros respetamos y defendemos

no le admito la interpretación porque vendría a ser tanto como decir que los socialistas no estamos defendiendo una paz con memoria una paz digna que no buscamos la disolución de eta sabe usted que eso no es así

y evidentemente entiendo que tampoco de ustedes y por lo tanto

cada uno tenemos nuestros momentos y tenemos que administrar los tiempos pero espero y deseo que una vez que se constituya la ponencia seamos capaces

cuando hablamos en su día hablamos que no acordamos que íbamos a proponer un texto muy sencillo por cierto señor barrio muy parecido

que podía ser una fórmula y qué hicieron ustedes a las veinticuatro horas

de las exigencias éticas del partido socialista y que significaba darles a ustedes la razón de que empezábamos desde cero y eso es deslealtad y eso es juego torticero y eso es aprovechar la buena voluntad para intentar llevar el agua a su molino y en esos términos es evidente que no se puede mantener ese compromiso porque si ustedes pretenden decir que un acuerdo de buena voluntad del partido socialista significa que yo me sumo a sus tesis parece

mínimamente y yo no les exijo a ustedes que acepten o no acepten ese texto pero tendrán que reconocer

y que hizo unas determinadas aportaciones y que concluyó con unas conclusiones que le ha leído el señor iturrate a los que creo que no se le puede poner tacha alguna y yo le digo desde ahora no voy a aceptar nunca

de que esto depende de un conflicto armado entre dos partes que provocó sufrimientos iguales en ambas partes porque no es cierto porque eso es a la realidad y falsear la historia y por eso hablamos de una memoria justa sí señora con memoria con reconocimiento de las víctimas evidentemente pero hay que saber cuál es el origen y el origen es una actividad terrorista que durante años ha matado

y lo que se propone en ese suelo ético y algo más lo defendían hasta hace cuatro días los señores que se sientan en esos escaños por parte de eusko alkartasuna o de alternatiba sin ningún problema

y con una exigencia mucho más alta por lo tanto no estamos planteando nada que no se haya discutido muchas veces en este parlamento muchas veces

un esquema de la historia que no se ajusta a la realidad de los hechos

entre dos partes enfrentadas aquí no ha habido un ejercito por un lado y otro por otro que han provocado muertos en ambas partes ha habido otra cosa mucho más seria

que anulaba la capacidad de ser críticos de tener otra visión del país y eso afortunadamente se ha acabado y yo le reconozco a ustedes los pasos que han dado cómo no se lo vamos a reconocer pero le sigue quedando una parte por hacer

ni que se pongan de rodillas pero sí queremos que ustedes asuman que lo que ustedes han venido defendiendo hasta hace tiempo

ha causado daño dolor y sufrimiento en este país y algo tendrá que ver eta en esa situación y habrá que recogerlo en el documento y será imprescindible que desaparezca

porque igual he entendido yo mal pero a mí me ha quedado la sensación de que cuando usted estaba hablando de lo que debiera o no debiera figurar en ese texto según su criterio

para mantener el fin de eta y para mantener la situación que tenemos ahora y la paz

gracias presidenta realmente no hay mucho más que añadir porque prácticamente todo lo que quería decir lo he planteado en mi intervención anterior creo que las posturas son claras y efectivamente los argumentos de upyd

claros son entendibles y se mantienen en el tiempo

con bastante asiduidad me refiero a la mayoría de los demócratas eso del suelo ético eso de los principios vamos a ver no tenemos claro los demócratas cuál es el suelo ético cuál es nuestro suelo ético no tenemos claro los demócratas cuales son nuestros principios no tenemos claro que los principios de los demócratas son la defensa de los derechos humanos

a las instituciones democráticas o el respeto a la legalidad vigente no tenemos claro esto hay que poner en marcha esta ponencia para defender estos principios

en absoluto nosotros defendemos y siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo estos principios defensa de los derechos humanos

y respeto a las instituciones democráticas que es justo lo que eta y los representantes políticos de eta aquí sentados han pretendido destruir

que ya los defendemos todos los días del año se pone en marcha para asumir

de la batasuna de toda la vida para hablar de sus cosas para hablar de presos para mezclar víctimas con verdugos para blanquear su historia esa es la pretensión que tiene eso que se llama la izquierda abertzale y no podemos entrar en ees juego esa es la pretensión que tiene y evidentemente claro que pone condiciones otra vez

claro que pone condiciones está poniendo condiciones desde siempre y las sigue poniendo encima de la mesa esa es la realidad

los demócratas pueden contar con upyd

impulsar los mecanismos del estado de derecho para derrotar a eta y para deslegitimar el terrorismo los demócratas pueden contar con upyd para eso pero insisto no cuenten con nosotros para asumir la agenda de eta ni para hacer la rosca ni para darle aire a eso que se llama izquierda abertzale aceptación mutua decía

no aceptación mutua no nosotros solo aceptamos y ustedes no lo son porque siguen justificando la historia de eta y siguen sin condenar a eta nosotros aceptamos a los demócratas a ustedes que no son demócratas no vergonzoso decía

y un ejercicio insultante de cinismo político que los representantes políticos de eta

a los ciudadanos es un insulto a los demócratas aquí presentes que somos mayoría ustedes representan la impunidad

impunidad ustedes representan la impunidad ustedes son la impunidad en estado puro

a darnos lecciones al resto de demócratas no vengan a darnos lecciones al resto de demócratas que insisto somos clarísima mayoría

condenen a eta reconozcan el daño causado hagan eso hagan eso antes que cualquier otra cosa luego nada no señora

luego justo lo que hasta ahora frente a ustedes

es decir defensa del estado de derecho defensa de la legalidad vigente defensa de los derechos humanos nada no todo esto

que quisieron acabar con todo esto y quieren acabar con todo esto durante décadas todo esto estado de derecho legalidad vigente respeto

efectivamente en esto se basa nuestra firmeza señor pastor es una cuestión de principios y seguiremos defendiendo estos principios siempre

decía el señor iturrate se sorprendía de nuestra posición

qué falta en esta iniciativa para que nosotros podamos asumirla pues mire lo que les falta es a ustedes les falta en este tema credibilidad

plenos que llevamos en esta legislatura nosotros entendemos que

en nuestra primera intervención se nota se nota mucho es decir da la sensación de que algo se mueve en relación con ese mundo que nosotros desconocemos y lo que queremos es sinceridad y se le pedimos a usted sinceridad díganos de verdad lo que hay

porque es que la enmienda transaccional

el parlamento vasco aprueba la constitución en una plazo de un mes de la ponencia de paz y convivencia

han sido incapaces incluso de decir que tomando como punto de partida

no solamente ya el hecho de la condena del terrorismo que nosotros exigíamos

en la enmienda de transaccional en la búsqueda de ese acuerdo el tomando como punto el acuerdo anterior las diferencias señor pastor

son constatables el acuerdo aquel que tomamos estaba

escueto pero estaba fundamentado en la sinceridad en la sinceridad de los grupos parlamentarios en la condena de los crímenes de eta la condena del terrorismo y eso se dijo aquí y eso lo dijeron todos esa izquierda abertzale que como he reconocido antes que se mojo y que lo dijo aquí hoy no

hoy hemos dado un paso atrás señor iturrate yo le respondo también a lo que preguntaba que qué es lo que pasa

el suelo ético mínimo es el suelo ético mínimo es que ha derrumbado se ha derrumbado

ético mínimo y algunas de las claves de eta han vuelto a parecer

en los planteamientos que se hacen ahora en relación con esta cuestión y eso es lo tremendo que nosotros podamos ser capaces de dejar una pista

no puede ser esa cuestión nosotros desde luego que compartimos y mantenemos y valoramos lo acordado

son exigentes los tiene que apoyar todo el mundo y en ese sentido pues cuando usted también no sé en un debate

la legislatura pasada nosotros hicimos lo que hicimos y estuvimos en la ponencia vuelvo a decir por las condiciones que se planteaba y por las garantías

qué ha pasado señora mintegi qué numerito nos ha montado usted aquí

otra vez para lo de siempre escenificando una posición patética

escapista otra vez para no responder al elemento fundamental otra vez

con una teatralización con una escenografía para volver a insultar

para volver a insultar a la policía democrática para compararlas con el gal para su discurso de siempre

de su discurso parece que de alguna manera ustedes están todavía bajo el control algunos de ustedes en sus discursos

hacen una escenografía una teatralización me parece patética verdaderamente en relación con estas cuestiones para luego escaparse por otro lado nosotros tenemos que decirle

en esta cámara que se mojó y desde luego la destruyeron ustedes

son un absoluto ético un todo prepolítico y no está sujeto al régimen de mayorías o minorías

en todas o en algunas de sus formas en este parlamento o en cualquier otro y existen y existirán y serán

en todas partes le gusten a la izquierda abertzale o no incluso le gusten o no a la mayoría de este parlamento o de cualquier otro

ha hablado que se trata de mirar atrás porque la última referencia que hacía en un medio de comunicación respecto a esta ponencia era que se trataba

hay que basarse en lo que ha pasado hay que mirar atrás para no repetir errores hay que mirar atrás

poder evaluar sacar conclusiones y construir un futuro firme

para no ser valiente no ser valiente usted y no ser valiente su grupo para no asumir el principio de responsabilidad mire por mucho que nos empeñemos reconocer el daño causado eso que ustedes han hecho ya en varias ocasiones ustedes como formación política y todas ellas asumir y el reconocer el daño causado es algo más que un enunciado incluso aunque se acompañe

es muy sencillo es decir solamente lo que se hizo estuvo

lo que pasó en este país estuvo mal matar a personas para imponer unas ideas estuvo mal gritar eta mátalos a quienes pedían en las plazas de los pueblos en la plaza de estación de algorta por ejemplo

o cualquier otra gritarles eta mátalos estuvo mal

señalar a personas perseguir a personas acusarles de fascistas de traidores

estuvo mal eso es reconocer el daño causado y lo demás es impostura

es intentar ocultar la responsabilidad de cada uno y es sobre todo intentar tapar y construir un futuro en base

si algo nos enseña la transición cualquier transición la española también es que tapando el pasado no se construye un futuro en libertad un futuro en concordia un futuro con futuro tapando el pasado no construimos el futuro hay que revisarlo hay que asumir las responsabilidades de cada uno

pretendernos hacer a todos comulgar con ruedas de molino nada más gracias eskerrik asko iturrate jauna

no es lo mismo múltiple que plural múltiple es aquella cosa igual que se repite varias veces plural es lo que acepta lo distinto lo que no piensa como uno como una se han acomodado en la multiplicidad aniztasuna da zuek

gracias presidenta voy a ir al grano en lo que se refiere a esta iniciativa planteada

está perfectamente explicada y como en otros asuntos obviamente ustedes

a qué es lo que finalmente van a votar no habrá posibilidad de que

pueda convencerles y como ya digo que los argumentos están claramente expuestos creo que voy a ser

esta iniciativa lo que propone es la reforma de las leyes electorales vascas en algunos de sus aspectos objetivos por un lado

electoral única en las elecciones al parlamento vasco esta ley

en las elecciones al parlamento cada uno de los tres territorios históricos siendo elegidos veinticinco parlamentarios por cada uno de ellos hasta alcanzar los setenta y cinco actuales estamos ante un sistema electoral que no respeta

creo que esto es algo objetivo y obvio que todos ustedes conocen puesto que los votos emitidos por los ciudadanos tienen valor distinto en función de la provincia donde residen el voto de un alavés por ejemplo vale casi cuatro veces más

proporcional ni justo en absoluto y por lo tanto nosotros lo ponemos encima de la mesa

la legislatura anterior la legislatura anterior también propusimos este cambio y ustedes

todos sin excepción votaron en contra volvemos a insistir creo que es una cosa fácilmente entendible y justa por otro lado pedir al gobierno vasco que promueva los cambios legislativos necesarios para el establecimiento de la circunscripción electoral única en las elecciones a cada una de las juntas generales de los territorios históricos

los votos de los ciudadanos valgan igual por tanto se trata de promover el cambio de las leyes electorales vascas para hacerlas más justas y proporcionales de modo que podamos cumplir el principio básico y esencial de todo sistema electoral democrático de la igualdad del sufragio esto es el igual

de los ciudadanos se trata en definitiva de superar la discriminación electoral del sistema actual y ganar en igualdad y proporcionalidad además proponemos la introducción de las listas abiertas para facilitar la autonomía de los elegibles ensanchar

y acercar a los representantes políticos a la ciudadanía las leyes electorales vascas definen las listas como cerradas y bloqueadas impidiendo una verdadera democratización de los partidos políticos es necesario impulsar

para reforzar la autonomía de los representantes respecto de las burocracias de los partidos políticos y para que los ciudadanos puedan elegir a sus candidatos de entre los propuestos por los partidos políticos sin atender necesariamente al orden impuesto por ellos

esta propuesta se entiende perfectamente un tercer asunto proponemos que concejales junteros alcaldes y parlamentarios vascos

cada cargo público un solo cargo público además de obviamente un único sueldo los ciudadanos se merecen que sus cargos públicos se dediquen enteramente a desempeñar las funciones para los que han sido elegidos y no

impedir la acumulación de cargos públicos para que también de este modo

savia nueva a la política se trata de evitar por decirlo claro que haya quien venga a este parlamento únicamente a votar porque realmente se está dedicando a otras cosas o incluso que no venga

a veces ha ocurrido finalmente proponemos perfeccionar la lucha contra la corrupción política esa gran lacra que existe en el conjunto de españa

los partidos viejos han venido evitando que nada

en nuestra opinión deben impulsarse una serie de medidas legales algunas ya han sido propuestas algunas del tipo de las que han venido botando en contra por cierto

deben darse en nuestra opinión dos requisitos para acabar con la lacra de la corrupción política por un lado

que los corruptos vayan a la cárcel y que los ciudadanos tomen nota de las actuaciones

público para que se deje de votara esos partidos políticos que no han hecho lo suficiente o no hacen lo suficiente para acabar con la corrupción política aquí

que posibiliten que los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni en su caso seguir ostentando cargos públicos tal como se dice obviamente sin perjuicio del respeto al artículo veinticuatro punto dos de la constitución resumiendo circunscripción electoral única listas abiertas que concejales alcaldes y junteros no puedan ser además parlamentarios y que

no puedan integrar candidaturas electorales ni en su caso seguir ostentando un cargo público esa es por tanto la propuesta que nosotros defendemos

como este tema lo hemos discutido ya en este parlamento hace unos meses y las

pero sabe usted y saben ustedes que el gobierno socialista anterior remitió a la cámara en la pasada legislatura un proyecto de ley

un proyecto que como es sabido no dio tiempo por la anticipación de la convocatoria de elecciones a que se pudiera discutir en este parlamento pero seguimos pensando como pensábamos entonces cuando asumimos la responsabilidades de gobierno que una ley de estas características resulta necesaria

a lo que es la realidad actual que ha ido cambiando y más concretamente para adaptarla a las reformas que se han ido introduciendo en la ley orgánica de régimen electoral general

y acuerdos y decisiones que ha ido adoptando el tribunal constitucional y es necesario también mejorar el texto legal en determinados aspectos de técnica jurídica cuestiones como por ejemplo algunas de las que usted hablaba determinación de causas de inelegibilidad en el parlamento limitación por parte de los poderes públicos de campañas

candidaturas clarificación de los casos de voto nulo o favorecimiento de la participación de personas con discapacidad visual o auditiva por citar algunas de las modificaciones que habría que establecer

que en materia electoral afine aún más las garantías que hoy tienen los ciudadanos para conseguir las máximas seguridades en el proceso electoral

de mesas electorales y por eso y en coherencia con las posiciones que hemos venido defendiendo instamos al gobierno vasco a que antes de finalizar el presente periodo de sesiones

de la misma forma que le instamos a seguir promoviendo mecanismos de participación y transparencia como los que pusimos en marcha en la anterior legislatura y de hecho hemos intentado realizar o llegar a un acuerdo de enmienda transaccional con el partido nacionalista vasco pero por desgracia al partido nacionalista vasco le ha perecido que no era conveniente ponerle un brete al gobierno exigiéndole

el acuerdo de transacción aunque en realidad en el espíritu general que ambos manteníamos creo que podíamos haber llegado

en cualquier caso esto es lo que nosotros pensamos que se debe hacer y otra cosa distinta es que como propone upyd nos metamos ya aquí y

en los contenidos que vaya a tener o no esta ley porque pensamos que no es el momento para decantarnos sobre cuestiones que además de las que he comentado antes

o la reducción del número de escaños o las listas abiertas por citar algunas de las más importantes de la pnl del señor maneiro porque creo que el señor maneiro conoce el país en el que vive

y conoce también el peso emocional que tienen todavía en este país los territorios y supongo que sabe que los cambios que propone introducir no se pueden hacer de la noche a la mañana porque sería un brindis al sol y quiero suponer también que el señor maneiro es consciente de que las leyes electorales especialmente las leyes electorales siempre tienen que ser productos del máximo consenso posible entre todos los partidos políticos y que por consiguiente los cambios que haya que introducir que son de gran calado

y de una gran capacidad de consenso entre las fuerzas políticas y sabe también que por decisión de este parlamento se va a constituir aquí en su seno una ponencia que va a analizar

el modelo institucional de euskadi para hacerlo más útil y eficaz al servicio de la ciudadanía y nos parece que este dibujo institucional sobre el que se va a hablar en esa ponencia algo tiene que decir también a la hora de abordar estos u otros cambios que se puedan introducir por eso en esta como en otras cuestiones no nos parece que sea lo más conveniente empezar la casa por el tejado vamos a dejar que trabaje la ponencia

que nos parece urgente y después y con las conclusiones que se aborden y se

los cambios legislativos que correspondan y en cualquier caso mientras tanto el gobierno puede perfectamente traer

modificada en el futuro y en esa segunda fase hablaremos de todo señor maneiro de lo que usted propone con lo que podemos estar de acuerdo en unas cuantas cosas y nosotros estamos abiertos a cualquier debate este partido que usted define como viejo el suyo es muy nuevo es evidente aunque alguna de sus dirigentes tiene unas cuantas décadas más pero en fin

por estar en posesión de algunas verdades que a otros se nos escapan tan claramente como usted nos quiera imponer como evidentes algunas tomas de posición
que cuando menos permítame usted puedan ser discutibles eskerrik asko pastor jauna

que es sencillamente una decisión disparatada y un menosprecio a los ciudadanos

aurkeztu dugun osoko zuzenketa porque entendemos que con la propuesta de upyd

ni con la irritación ni tampoco con su indiferencia y entendemos que para que los ciudadanos recuperen su confianza en la política y en la administración

actual cultura de organización se trata de ir cambiando la cultura de que el ciudadano se tenga que ajustar a los requerimientos de la administración

sobre la base de buscar la mejor forma de satisfacer las necesidades de la ciudadanía se trata de configurar una administración cercana a la ciudadanía

y establecer mecanismos permanentes de diálogo negociación y acuerdo con la ciudadanía sobre las decisiones más importantes que le atañen directamente

siempre como base la transparencia para que las personas estén bien informadas en todo momento de las políticas públicas eta bukatzeko

señorías señor maneiro el sistema electoral a nuestro juicio es una pieza clave

ordenamiento jurídico pero no hay un solo sistema electoral democráticamente admisible la verdad es que

cuentan con leyes electorales diferentes con un tratamiento distinto en función de cada caso de la proporcionalidad de la representatividad y de los diferentes elementos que deben a juicio de todos contribuir

no dificultarla y hay muchas leyes y hay diferentes ejemplos en nuestro entorno se han de buscar a nuestro juicio desde luego las fórmulas que mejor se adapten a cada realidad pero hay que hacerlo siempre buscando el consenso hay que hacerlo buscando modelos aceptados por la mayoría modelos acordados que garanticen una continuidad en el tiempo lo que es

lo que es inaceptable es generar inseguridad e incertidumbre en lo que significa una pieza clave de nuestro sistema democrático y hacer leyes a la medida o

que tengan una connotación de interés puramente coyuntural una ley electoral forma parte para nosotros del núcleo de la democracia por eso requiere consenso y porque

una ley electoral establece las reglas del juego democrático y esto no se puede abordar con esa frivolidad con la que usted trae este asunto a la cámara es que no es admisible afrontar una modificación electoral

upyd sí en estos años aquí en esta cámara en otras cámaras autonómicas y también en las cortes generales desde la demagogia y desde el oportunismo proponiendo

señor maneiro proponiendo una cosa distinta en cada sitio lo que nos presenta hoy

de promover algún cambio electoral en la dirección que usted ha explicitado aquí

una iniciativa legislativa no una proposición no de ley claro hubiese traído aquí

claro pero usted no pretende cambiar nada usted pretende titulares usted pretende siempre como siempre en este tiempo tratar además de deslegitimar

básicamente no puede haber en nuestro juicio sistemas electorales a la medida como usted plantea a la carta no puede haber desde luego como le decía modificaciones electorales coyunturales o a la medida de cada uno aquí ya se planteó una modificación electoral a la medida de

le recuerdo que aquí el pnv pactó con el señor madrazo a cambio

una modificación a la medida de en aquel caso a la medida de izquierda unida y del señor madrazo que era rebajar del cinco al tres por ciento el

de la exigencia para tener representación

mayores oportunidades de conseguir escaños en los tres territorios históricos eso fue una modificación a la medida

por eso a nosotros nos parece que una ley electoral no puede reformarse a golpe de ocurrencia y que nos venga usted hoy aquí a

le han dicho que les conviene a ustedes aquí y que en otros sitios en cambio proponen cosas distintas sí nos presenta una proposición que no tiene valor legislativo y que además lo mezcla todo es un totum revolutum

a entrar a discutir cada uno de los asuntos que trae aquí sí usted trae una proposición que lo mezcla todo mezclan afecciones estatutarias porque plantea

única que usted plantea además de suponer un ataque a nuestra propia singularidad como comunidad sí es un ataque frontal a nuestra propia singularidad

quiere cargar su representación de un plumazo es un desprecio a los territorios históricos pero es que además en concreto especialmente especialmente perjudica a álava usted sabe perfectamente que su propuesta especialmente perjudica a araba y a los alaveses

de los que usted se ha servido para estar aquí sentado aunque usted casi no pise álava

a los que hoy trata usted de perjudicar con su propuesta con un desprecio absoluto a nuestra propia singularidad y le voy a decir algo más es que además de plantear aquí propuestas que exigirían modificaciones estatutarias

trae propuestas que exigen que afectan a otras leyes la ley de elecciones al parlamento vasco y también la ley de las elecciones a las juntas generales creo desde luego esa proposición no de ley lo que denota es una clara intención de provocar un debate vacío sin ninguna intención de verdad sincera de promover un debate que busque el acuerdo con nadie lo hace yo creo que tratando de engañar a la ciudadanía porque hombre que usted venga aquí con toda la cara a plantear una reducción de escaños es algo que nosotros llevamos en el programa y que no tenemos ningún problema en discutir si esta cámara tiene que

estamos dispuestos a analizar y a discutir pero que usted traiga aquí una propuesta de reducción de escaños cuando su partido

lo que ha defendido es aumentar de trescientos cincuenta a cuatrocientos los escaños si hemos tenido que

diciendo que le parecen pocos trescientos cincuenta escaños en las cortes generales porque

y cuatrocientos noventa los franceses y qué hacemos nosotros solo con trescientos cincuenta que ella quiere cuatrocientos

nos viene a proponer una reducción de escaños y en asturias qué ha hecho upyd claro no le puede hablar de todas las comunidades autónomas porque usted no está ustedes no están qué hacen ustedes donde tienen la responsabilidad de mojarse en asturias se planteó una reducción de escaños de cuarenta y cinco a treinta y cinco hace poco

upyd se opuso a la reducción de escaños en asturias entonces usted qué viene aquí a contarnos

como en tantas ocasiones upyd lo que está tratando es de sembrar desconfianza y descrédito

de ultima hora en el partido que seguramente igual son los que están en este momento pesando más en estas posiciones

de sembrar dudas entre los ciudadanos sobre nuestras propias instituciones democráticas sembrar el descrédito sobre todo

upyd con un desde luego un ataque frontal a lo que somos como comunidad a lo que significan nuestros territorios históricos y desde luego con un ataque frontal a los alaveses

cuando ustedes han impuesto a sus militantes alaveses que usted sea el candidato por álava

los alaveses los que encabecen su propia candidatura nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna eh bildu taldearen ordezkaria den maeztu jaunak dauka hitza

o incluso insultan como en el caso del señor oyarzabal a falta de argumentos insultan sí insultan

la realidad y hacen un ejercicio de provincialismo rancio y penoso a estas alturas del siglo veintiuno

la señora otadui ha dado argumento y ha explicado su posición otros

o de falangismo también ahí yo creo que se ve el nivel de cada uno lo que está claro es que ustedes no quieren impulsar ni uno solo de estos cambios

ustedes no quieren la circunscripción electoral única porque siguen manteniendo

ustedes no quieren introducir las listas abiertas para seguir controlando sus afiliados y a sus candidatos ustedes no quieren que alcaldes concejales

parlamentarios vascos y no quieren luchar como suponíamos contra la corrupción política por cierto el último de los puntos clavado a una reciente iniciativa planteada en el congreso de los diputados firmada por el partido popular por el partido socialista y por upyd si quieren ustedes podemos votar por puntos para que al menos ese punto puedan votarlo a favor y no hagan gala otra vez de una incoherencia absoluta

no me pongan ustedes problemas técnicos esta cuestión es cuestión de voluntad política si se quieren acometer estos cambios o no se quieren acometer estos cambios y ustedes obviamente no quieren acometer estos cambios pero no pongan problemas técnicos

habrían ustedes votado en contra hay que reformar las leyes electorales qué problema hay hay que reformar el estatuto de gernika para que esto sea posible

y qué problema tienen ustedes no me pongan ustedes problemas técnicos es cuestión de voluntad política

señor pastor no es el momento de decantarnos decía usted hombre mójese un poco más diga de acuerdo con alguno de los puntos en lugar de decir que hay que traer la reforma de la ley electoral con cuáles de estos puntos estaría usted de acuerdo díganos mójese dice que la iniciativa es precipitada

se tendría que haber planteado mucho antes nosotros la planteamos no hace unos meses hace algunos años y seguiremos trayéndola a este parlamento aunque nos quedemos solos porque consideramos que estos cambios son perfectamente posibles y necesarios sí para regenerar la democracia que buena falta hace y para luchar contra la corrupción política

y haya el mayor consenso posible pero el consenso depende más bien de ustedes que de nosotros nosotros somos solo uno con lo cual difícilmente podemos defender o hacer posible el máximo consenso posible si ustedes realmente lo que hacen al final es votar en contra

pero ustedes están en contra de todas estas iniciativas por lo tanto defiendo cada una de ellas yo creo que es un menosprecio a los ciudadanos hablaba el señor oyarzabal de

una propuesta antidemocrática y un menosprecio a los ciudadanos yo creo que es un menosprecio a los ciudadanos por ejemplo no poder asistir a plenos como ha ocurrido

hoy mismo por la mañana eso sí que es un menosprecio al ciudadano es decir que haya determinados parlamentarios que no puedan acudir a los plenos del parlamento vasco

que alcaldes junteros concejales no puedan ser parlamentarios vascos me parece de sentido común obviamente ustedes votan en contra nosotros sí creemos estamos convencidos de que estas medidas son medidas de regeneración democrática

la política a los ciudadanos indispensables por supuesto otras también habría que habilitar

indispensables no es ninguna broma señor oyarzabal qué habla usted de frivolidad

de tomadura de pelo por qué es una propuesta que defienden miles y miles de ciudadanos en euskadi y en el resto de españa estas mismas propuestas que haya una ley electoral que sea proporcional que haya listas abiertas que se luche más

contra la corrupción política dice que deslegitima el sistema democrático

que no pueden asistir a los plenos porque están en otro lugar eso sí es deslegitimar el sistema democrático y una falta de respeto

habla de desprecio a los territorios históricos lo que no hay que hacer es despreciar a los ciudadanos esta es una iniciativa pensada en los ciudadanos no pensada en upyd pensada en los ciudadanos

usted ha hecho gala de un provincialismo absolutamente rancio descrédito de posición antidemocrática la de upyd yo creo que la verdadera posición antidemocrática es

proteger a los corruptos por ejemplo señor oyarzabal maneiro jauna

proteger a los corruptos es una posición antidemocrática y un insulto a los ciudadanos indultarlos

a los ciudadanos o repartirse sobres eso también es un insulto a los ciudadanos plantear propuestas para modificar leyes injustas para que esas leyes puedan ser mejoradas luchar mejor contra la corrupción y acercar la política a los ciudadanos

sino todo lo contrario efectivamente este asunto

hace algunos años hace dos o tres años volveremos a plantearlo tantas veces como sea necesario pensamos que es indispensable impulsar

todas las reformas legales que sean necesarias para que se impulsen estos cambios y otros y desde luego luchar contra la corrupción política en lugar de proteger a los corruptos

ha traído soflamas ha traído una proposición no de ley que sabe perfectamente que lo que buscaba era el desencuentro

iniciativa en aras a modificar una ley electoral y la verdad que usted quiera renovar la política

más de treinta por lo menos nos va a venir a dar lecciones

bajar aquí otro día y aprovechar para explicarnos qué hizo rosa diez cuando

en la historia de la democracia en el país vasco que tenía que ver con la sanidad

lo que en aquel momento hizo rosa díez ningún recuerdo pero me gustaría que en la próxima intervención usted me explique qué es lo que hizo rosa díez

con aquellos que se vieron salpicados por aquel escándalo en todo caso le vuelvo a repetir su iniciativa es un ataque a los alaveses es un ataque a los territorios históricos

usted nos viene a hablar aquí de que a inventado la pólvora upyd

que mejor recoge la proporcionalidad de los países de nuestro en torno sí el mejor

en otras las minorías quedan barridas por el sistema mayoritario aquí no

que protegen a las minorías y que protegen también a aquellos territorios menos poblados para recoger además también

de esos territorios y usted que está aquí sentado en nombre de electores alaveses trae aquí una propuesta que le perjudica a los alaveses sí usted está aquí sentado y representa es usted

y upyd en este momento está atacando el interés de los alaveses y eso es verdad

que lo hubiese contado usted en vitoria y en álava los pocos ratos que se paseo por aquí

que quiere listas abiertas no sé para qué para respetar la voluntad de qué afiliados si para que usted pueda ser parlamentario ustedes han impuesto a sus afiliados alaveses que sea usted el candidato aquí

la voluntad de qué afiliados ustedes no tienen legitimidad para esto porque ustedes lo que buscan simplemente son propuestas demagógicas que tratan de sembrar dudas y descrédito en nuestras instituciones y desde luego en el conjunto de la política para ver si a río revuelto pescan ustedes algo ustedes desde luego prestan un flaco favor a la democracia

hágalo en serio y no traiga aquí bromas y desde luego lo que yo quiero anunciarle es que el grupo popular está dispuesto a abrir

y desde luego a fortalecer acuerdos en relación con el número de nuestros representantes en esta cámara en relación también con cualquier otra cuestión que tenga que ver con situación de acusados por corrupción y todas las cuestiones

para tratar de conseguir algún titular de prensa en una absoluta incoherencia con lo que hacen ustedes allí donde tienen representación de momento es en pocos sitios creo que tienen representación en tres sitios y ya

catorce incoherencias entonces imagínese el día que ustedes tengan representación en todas partes no va a ver dios quien se aclare porque ustedes en cada sitio dicen una cosa

a día de hoy tienen muy poca credibilidad para traer propuestas de esta naturaleza

oso gutxi berritu al duelako rosa díez ek guretzako porque una persona

sueldos públicos y que un miembro de ese partido del partido de rosa díez nos venga aquí a dar

que está totalmente fuera de lugar pero es que además que esa persona destituya a los dirigentes de su partido como ocurrió en aragón

listas abiertas y usted nos venga aquí a hablar de listas abiertas el problema es que usted venir aquí a hablar de lo que quiera pero

tras tema de darnos lecciones de lo que podemos y no podemos hacer los demás de lo que somos y no somos los demás